pero hay un principio en derecho internacional que se formula con la

es decir o se extradita o se juzga un estado que tiene conocimiento de la existencia de perpetradores de delitos

opera el problema es que el reino de españa ni extradita ni juzga los delitos de lesa humanidad acontecidos durante el franquismo

aquellos mecanismos de naciones unidas solicitaron que se tomara acción y decían además que se debía de hacer antes del veinticinco de noviembre de dos mil catorce nada silencio por parte del gobierno

en otro debate hoy se hablaba de criticar decisiones

aquí en este caso se obvian explícitamente se elude cumplir con estas decisiones nuevamente muestra del tesón e importancia que estos organismos internacionales otorgan al tema el pasado veintisiete de marzo cuatro relatores y expertos de naciones unidas reiteraron esa solicitud en un documento que se titulaba españa debe extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos anunciaban el estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos

de las víctimas ante las instancias legales españolas hacían esta decisión la hacían pública tras aquella otra decisión que había sido adoptada por el consejo de ministros de rechazar la extradición de diecisiete ciudadanos españoles imputados por la comisión de crímenes internacionales durante el franquismo y reclamados por la justicia

en el ejercicio del principio de jurisdicción universal remarcaban que conforme a derecho internacional ese

sobre el reino de españa los crímenes tales como desapariciones forzosas ejecuciones sumarias arbitrarias

son crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles y nos susceptibles

así pues nos encontramos con un problema jurídico al que se une además un problema político

lo representa la ley de amnistía de quince de octubre de mil novecientos setenta y siete que actúa como un verdadero tapón como

para que se pueda cumplir esta obligación internacional el problema político

de la falta de voluntad política para buscar caminos que permitan

estas recomendaciones dificultad jurídica y falta de voluntad política que además tiene responsables

el pp quien hace omiso a las responsabilidades internacionales es el pp quien niega la verdad la justicia la memoria a estas víctimas es el pp quien quiere un escenario de absoluta impunidad para los perpretadores de crímenes de lesa humanidad o genocidio durante la dictadura franquista

en este país se han perpetrado miles de delitos de desapariciones forzosas miles de ejecuciones sumarias

en circunstancias de represión política de persecución social cultural en situación de coerción sistemática y generalizada el franquismo esas víctimas tienen nombres y apellidos esos delitos son imprescriptibles y no susceptibles de amnistía así lo reconoce la legislación internacional así lo reclaman los organismos que velan por su respeto así lo ha visto un juzgado

un estado con gran bagaje y sensibilidad para cuestiones de memoria verdad y justicia un país en el que se ha instaurado la memoria y la justicia podemos concretar más los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad están identificados y además se conoce su paradero como sus víctimas los autores de estos crímenes tienen nombres y apellidos así es el caso de los ex ministros josé utrera molina y rodolfo martín villa

por la matanza del tres de marzo aquí en gasteiz no voy a versar sobre las conexiones familiares y políticas de ambos por ser obvias la interpol también solicitó la detención y extradición a argentina el pasado cuatro de noviembre del ex policía josé antonio gonzález pacheco

torturador bien conocido por militantes políticos vascos o el ex guardia civil jesús muñecas famoso aquí por practicar torturas entre otros a andoni arrizabalaga itziarren semea los militares josé maría sánchez ventura pascual fernando suárez

son reclamados por su parte por haber firmado la sentencia de muerte de juan paredes txiki

y reconocidos ahora por medio del decreto de víctimas de vulneraciones de derechos humanos aquí pero sin posibilidad de obtención de justicia como podemos verificar como digo conocidos identificados localizados el gobierno de españa aporta y ofrece refugio a estos torturadores a estos asesinos la policía española desoye

la fiscalía mira para otro lado los tribunales se dicen incompetentes consecuencia en este país se da protección se da refugio a criminales

delitos internacionales el franquismo sus ejecutores están protegidos por un manto de impunidad están instalados

mientras permanezcan en territorio español nada sucederá ekimen hau ekartzen genuen eguneratu dugu eta

sí gracias presidenta asuntos previos indispensables que merecen la pena señalar antes de entrar en el meollo de la cuestión

llama la atención su hipocresía política y su cinismo político cuando habla de estas cuestiones

trata de mostrar cierta preocupación aunque sea impostada por las víctimas del franquismo de hace décadas pero sin embargo guarda absoluto silencio en relación

lo cual evidentemente deja en evidencia su cinismo y su hipocresía política que por cierto ha sido ampliamente demostrado por usted mismo

y esto es lo primero que cabe señalar por un lado se muestra dispuesto a hacer justicia en todo lo que se refiere a las víctimas provocadas por el franquismo pero sin embargo sigue a día de hoy jaleando

una banda terrorista cuya disolución sigue sin exigir una banda terrorista a la que no pide que no se disuelva y a una banda terrorista a la que no exige las armas por lo tanto en primer lugar cabe destacar su inmensa hipocresía y su cinismo político absolutamente insoportable en segundo lugar usted habla de la guerra de mil novecientos treinta y seis es decir evita llamar guerra civil a la guerra civil española

una guerra civil entre españoles por mucho que usted pretenda manipular la historia de fascistas contra demócratas pero guerra civil al fin y al cabo en tercer lugar usted dice que el estado español cuenta con una de las mayores cifras de desapariciones forzadas del mundo y no es exactamente así en todo caso serían desapariciones forzadas provocadas por el régimen franquista que se alzó contra legítimo gobierno

repasemos aunque sea sucintamente los hechos históricos y hagamos una breve cronología de lo que ha ocurrido durante las últimas décadas desde el alzamiento fascista pasando por la guerra civil la represión franquista la dictadura los crímenes y la ausencia de libertades

la transición pero también la ley de amnistía la ley de memoria histórica y en los últimos tiempos la pretensión de algunos de traer rencores por simples intereses partidistas el golpe de estado de julio de mil novecientos treinta y seis fue una sublevación militar dirigida

surgido de las elecciones de febrero de aquel año y cuyo fracaso parcial condujo a la guerra civil española y derrotada la república al establecimiento de la dictadura de franco que se mantuvo en el poder

en mil novecientos setenta y cinco por tanto se produjo un alzamiento fascista y antidemocrático contra un gobierno legítimo que ha sido reiteradamente condenado

y a partir de ahí evidentemente lo que sabemos la cruenta represión la vulneración de derechos básicos y de las libertades ciudadanas la dictadura

solidaridad y apoyo y también la lucha por las libertades democráticas y el compromiso contra la dictadura y en favor de la democracia de miles de españoles en mil novecientos setenta y siete se aprueba la ley de amnistía

la ley fue considerada necesaria y positiva para el asentamiento de la democracia con el paso del tiempo su significado cambió para algunos y digo que para algunos y a partir de ahí se han planteado incluso peticiones de derogación de esta ley de amnistía que seguimos defendiendo nosotros seguimos defendiendo la ley de amnistía un importante sector político jurídico y de opinión pública donde se sitúa upyd sigue considerándola como un logro de la oposición democrática al franquismo

la larga confrontación sufrida por los españoles desde mil novecientos treinta y seis en julio de dos mil once

presentó en el congreso de los diputados una proposición para derogar la ley y la propuesta fue rechazada por una amplia mayoría formada por partidos de diversas ideas políticas

y ocho abstenciones el partido socialista obrero español resaltó que la ley fue la forma de superar las guerras civiles y que el olvido era recíproco para ambos bandos

hizo hincapié en que la ley de memoria histórica ya había reconocido la ilegitimidad de los tribunales franquistas el partido popular expresó su apoyo a la misma y reprochó a los partidarios de su derogación que volvieran

y el partido nacionalista vasco por su parte consideró aquel debate como irrelevante nosotros defendemos la ley de amnistía

no hace demasiado escribía el historiador santos juliá la ley de amnistía de octubre de mil novecientos setenta y siete quiso simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia que algunos parece ser que quieren romper

el pasado al presente pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia a la pregunta de si fue la ley producto

o causa de un olvido responde este historiador que en absoluto no impuso una tiranía

y señala sus objetivos los objetivos de aquella ley de amnistía sacar de la cárcel a todos los presos de eta y a cambio extender al amnistía a autoridades funcionarios y policías

en mil novecientos setenta y siete señalaba que había que amnistiar el pasado de todos para construir un país nuevo en el que todos podamos

un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil antes de ella en ella y después de ella

en palabras de julio jáuregui representante del partido nacionalista vasco evidentemente cabe recordar también las palabras y la intervención del diputado comunista marcelino camacho

de mil novecientos setenta y siete decía cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado

la amnistía decía es una política nacional y democrática la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas queremos abrir

queremos cerrar una etapa queremos abrir otra decía marcelino camacho y evidentemente también desde el año dos mil siete tenemos la ley de memoria histórica que nosotros reivindicamos y apoyamos una ley que prevé medidas para que las administraciones públicas faciliten

a quien lo solicite tareas de localización e identificación una ley que amplía las cuantías de las indemnizaciones percibidas que declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas que establece medidas para eliminar símbolos del franquismo o que amplía a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad española en el exilio la posibilidad la recuperen una ley que sirve para hacer justicia para compensar y para investigar y que reconoce el derecho a la memoria personal y familiar

y queremos poner en valor y pedir además que se siga desarrollando y tenga un mayor alcance recorrido e impacto que el que en los últimos años ha tenido esto es por lo tanto lo que nosotros defendemos

los decretos que se han aprobado para restituir derechos de los represaliados desde los militares que lucharon junto a la república hasta los llamados niños de la guerra pasando por los que perdieron su condición de funcionarios públicos y también en euskadi se han llevado a cabo actuaciones ciertamente interesantes que nosotros valoramos y ponemos absolutamente en valor seguramente no sea suficiente y haya que hacer muchas cosas

de memoria histórica por lo tanto en conclusión y para terminar defiendo la lucha por las libertades de los antifranquistas no de los de ahora sino sobre todo de los de entonces defiendo la transición española

y errores defiendo la ley de amnistía defiendo el discurso de marcelino camacho y defiendo la ley de memoria

ser de verdad aplicada y que ciertamente los últimos tiempos no ha tenido excesivo desarrollo y en definitiva defiendo la enmienda que hemos registrado queremos que este parlamento recuerde la vigencia y que ponga en valor y haga suya

durante la guerra civil y la dictadura e instar al gobierno vasco a mantener e intensificar las acciones dirigidas a recuperar y honrar la memoria de quienes padecieron el alzamiento fascista la cruenta guerra civil y la dictadura franquista así como al conocimiento de nuestra historia reciente y al fomento de la memoria
por lo tanto esta es la enmienda que nosotros apoyaríamos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

más de medio año desde que se presentó esta iniciativa en el registro de la cámara

ha variado sustancialmente con lo que se planteaba inicialmente se ha pasado de reclamar la verdad justicia y reparación que merecen las víctimas de las desapariciones forzadas por el franquismo a instar al gobierno español a que se acceda a las órdenes de detención

de diversas personas imputadas por crímenes

dictadura franquista para ponerlas en manos de la justicia argentina mas allí de la desorientación

quiero en principio manifestar que nuestro grupo comparte desde un punto de vista moral todos los argumentos que aquí se den de denuncia de los crímenes del franquismo seguimos revindicando

justicia y reparación de las víctimas de una guerra provocada por quienes se levantaron contra un gobierno legítimo de las víctimas que produjo la dictadura instaurada por los vencedores verdugos de aquella guerra y de todas la víctimas que se han producido

en fechas más recientes en la enmienda que hicimos en su día y que hoy vamos a mantener instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo las acciones necesarias

a las víctimas de la guerra civil y del franquismo pensamos que nuestra legislación existe una herramienta absolutamente eficaz para desarrollar esa labor

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura muchas de esas víctimas han visto reconocidos sus derechos por efecto de la ley que he mencionado tenemos un marco mediante el cual se pueden hacer justicia reconocer y rehabilitar

somos conscientes de que el gobierno del pp está poniendo todas las trabas posibles para el desarrollo de esta ley

de su desarrollo y una frustración de las víctimas con las que nos sentimos solidarios porque estas víctimas tuvieron que esperar demasiado tiempo para verse reconocidas los socialistas apostamos por recuperar la ley

por adaptarla si es necesario queremos devolver la actividad que se desarrolló entre los años dos mil ocho y dos mil once años en los que se vieron ampliados los colectivos como los guerrilleros o brigadistas a los que se les reconoció los derechos como luchadores

se mejoraron las cuantías de indemnización a percibir se financiaron investigaciones históricas y
la apertura de isiltasuna mesedez paralelamente a esta vía política hoy se nos plantea la vía penal que

pero que si no se ha llevado a cabo es porque los que han decidido son los tribunales españoles han sido la audiencia nacional

y varios juzgados de primera instancia quienes han examinado la cuestión y quienes han concluido que no es posible la extradición que hoy se está planteando han sido los tribunales los que han decidido que se debe aplicar la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete son ellos los que han planteando que la obligación de los estados firmantes de los acuerdos internacionales no puede alcanzar retroactivamente hechos cometidos

por eso el consejo de ministros el trece de marzo de este año denegó la extradición basándose en estos informes jurídicos

estamos pues ante una decisión basada en fundamentos jurídicos más que ante una postura política

al partido popular en el poder los socialistas no renunciamos a seguir intentando la vía penal

creemos que deben reforzarse las vías políticas y vuelvo a apelar a devolver a la llamada ley de memoria histórica su protagonismo mejorarla incluso para que cubra todos los vacíos que puedan detectarse seguimos defendiendo a las víctimas

queremos proclamar la superioridad moral de las víctimas sobre los verdugos

no vamos a votar a favor de la enmienda transaccional que han formado los grupos pnv y ehb nos abstendremos y vamos a mantener nuestra enmienda

el derecho de todas las víctimas a la verdad justicia reparación y garantía de no repetición pero de todas las víctimas de las víctimas de la guerra civil de la dictadura del terrorismo y de los contraterrorismos ilícitos esa va a ser nuestra posición

no ha cumplido con una resolución internacional y lo que vamos a discutir hoy lo podemos basar en dos fuentes la primera está dentro del programa base de prioridades dos mil quince dos mil dieciséis en materia de memoria histórica

para la paz y la convivencia y en segundo lugar tenemos también en el ámbito internacional la principal referencia de derecho internacional es la resolución sesenta barra ciento cuarenta y siete de la asamblea general de las naciones unidas de diciembre del año dos mil cinco que dice que se aprueba el documento principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones y manifiesta su derecho internacional humanitario

en resumen estamos hablando de cuatro puntos que creo que todos estamos de acuerdo que es la reparación de la verdad la justicia la compensación y también el derecho a la garantía de no repetición en el estado español todavía existen

junto a los cementerios y en las cunetas de las carreteras que están sin exhumar y también cuantificándolo en un término medio puede haber ciento cincuenta mil personas

esperan un reconocimiento como tales víctimas problemas judiciales y problemas políticos aparte hay que recuperar la verdad

a contar un relato verdadero también hay que hablar de la justicia la justicia que supone la superación del estado de impunidad de los culpables

una impunidad para los culpables las víctimas y sus familiares no pueden

también tenemos que hablar de una compensación digna en los ámbitos

y por último también debería haber los suficientes cambios jurídicos institucionales y sociopolíticos que aseguren la garantía de no repetición yo creo que

normal y firmable por todo el mundo dice así el parlamento vasco tomando en consideración la legislación internacional de derechos humanos insta al gobierno de españa a que acceda a las ordenes de detención preventiva y posterior extradición a argentina

de las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista

vayan a buenos aires para que se les tome simplemente declaración esta propuesta que vamos a votar positivamente

yo creo que habría que extenderla señor unzalu yo creo que usted está

cuando hablamos de verdad y justicia el asunto el fondo de la cuestión es tan grave que yo creo que las formas hay que dejarlas un poco hacia atrás usted hablaba de que ha habido un problema

evidentemente tenemos que dejar todos los temas formales y concentrarnos simplemente en el fondo yo

revolviéndose en su tumba y viendo con horror como ochenta años después sus compañeros socialistas de euskadi se inhiben y no votan a favor de una propuesta que es lógica y que podría votarla cualquiera y que yo creo que deberían también votarla

ninguna razón que ampare el que ustedes no voten positivamente esta

en este momento la actitud del que fue presidente de su partido en relación con este debate no lo sé

ahora a esas cuestiones no lo sé es una pregunta que usted se tiene que hacer y que nos la tiene que contestar en relación con esta cuestión

sarcasmo político del señor arzuaga pues vuelve a traer una iniciativa a este parlamento

parece que le preocupan algunas cosas pero otras no propugna cuestiones

y mucho menos practica pide actuaciones y responsabilidades incluso cronogramas de actuación a los demás y no ve las suyas sus responsabilidades sus asignaturas pendientes sus ataduras con eta y con las consecuencias de su colección de desapariciones y de crímenes y de asesinatos esta

defensor habitual de la intolerancia y del totalitarismo

representa eta el franquismo y la dictadura franquista han sido condenados por todos nosotros por todos los demócratas en este país

el fascismo y la degeneración que ha representado su banda de referencia señorías

la simplificación que el proponente nos plantea aquí hay un debate jurídico y de legalidad de calado que afecta además a los pilares de nuestra transición de nuestra convivencia democrática está claro

institucional surgen debates jurídicos que hay que fundamentarlos en las normas en las leyes en los acuerdos democráticos en los tratados en los acuerdos entre las

realizó un informe que ha sido analizado que ha sido estudiado también contestado por la representación del estado en términos jurídicos y de representatividad democrática ligados a la legalidad

y desarrollado en ámbitos posibles jurídica y legalmente ahora en función de un buen número de iniciativas parlamentarias tramitadas en el congreso de los diputados

sobre su posición sobre el informe y sobre los pasos que se están dando para cumplir las recomendaciones que no van contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad

españa agradecía la visita del grupo de trabajo

en respuesta a una invitación abierta y permanente que se extendió en dos mil uno a todos los procedimientos especiales

multilateralismo y con el sistema universal de protección de los derechos humanos españa su gobierno ha agradecido al grupo de trabajo las recomendaciones y ha dicho

como suele ser el caso con los procedimientos especiales de las naciones unidas algunas recomendaciones se comparten otras se han empezado a aplicar y sobre todo

como se tuvo ocasión de explicar al presidente del grupo de trabajo en la sesión veintisiete del consejo de derechos humanos el pasado día doce de septiembre del año dos mil catorce

agradeció expresamente la colaboración de españa y su posición sobre los asuntos objeto de su mandato esas son algunas de las cuestiones que están sobre la mesa efectivamente con esa voluntad de asumir de desarrollar o de discrepar jurídicamente y legalmente de algunas de las cuestiones que se planteaban en la intervención del gobierno de españa

en la contestación al informe se dijo que una cosa importante y básica para todos nosotros

lo que tenemos y lo hemos conseguido bueno que la transición española

especial porque constituye un caso de reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias elegidas

y democracia justicia y reconciliación se encontró en españa a costa de renunciar a la justicia penal

para los derechos de las víctimas culminando con la adopción de la conocida como ley

en dos mil siete que aglutina medidas de reparación y reconocimiento así como de carácter simbólico

del consenso político en la transición estos elementos están igualmente presentes adopción de la ley de amnistía de mil novecientos setenta y siete que merece la especial atención del relator y que se agradeció especialmente al relator que haya examinado esta ley con mayor rigor

algunas cuestiones fueron analizadas en algunas se podía discrepar pero bueno eso es las cuestiones jurídicas

un alto grado de consenso sobre la extinción de la responsabilidad penal de los opositores a la dictadura pero que se debatiera la extinción de la responsabilidad penal de los defensores de la dictadura al contrario tanto

existen múltiples referencias al convencimiento de que solo a través de esta fórmula era posible la reconciliación es más

las actas del sexto congreso del partido comunista de españa entonces ilegal recogían la propuesta de la amnistía general

de la ilegalidad por parte del partido comunista de españa

de referencia y en esa posición el gobierno de españa decía que

otorga a la interpretación que el poder judicial ha dado en españa al principio de legalidad

nuestro planteamiento también en este debate nosotros estamos con los pronunciamientos de los tribunales españoles

ha de ser aplicada interpretada con exquisita observancia del principio de legalidad y sus manifestaciones de lex previa cierta

es por ello erróneo calificar peyorativamente como interpretación formalista la aplicación por los jueces de dichos principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal pilares por otra parte del estado de derecho y del estado democrático bueno son cuestiones que que se plantean como posición política pero como debate jurídico también y que desde luego nosotros compartimos otras preguntas parlamentarias también se han referido de una manera efectiva en una pregunta parlamentaria al señor centella en el congreso de los diputados se decía que el informe del relator de naciones unidas sobre la promoción de la verdad la justicia la reparación

constatación de que la puesta en práctica de medidas de verdad justicia reparación y garantías

complejidades peculiares ya se hablaba de esa cuestión en relación con el informe reconoce sin embargo que la consolidación de la democracia

constituye uno de los logros insignes de la transición española señala además que la consolidación de la democracia robusta y estable es en sí misma un instrumento para garantizar la no repetición

y solo leen lo que les interesa o lo que no les interesa vamos

tuvo la ley a la que nos hemos referido antes y ese papel clave que desempeñó en transición de la democracia son esas las cuestiones que nos llevan a votar en contra de la enmienda

apoyar las enmiendas de totalidad del partido socialista y de unión

y democracia pero está claro que el frente

de la simplificación y el rodillo de la confrontación desde luego que

de la enmienda de transacción ya que nos alineamos con los pronunciamientos realizados por la justicia española muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

para los casos que estamos hoy tratando impone el olvido por decreto no es esa mi voluntad nunca ha sido y nadie me habrá escuchado que sea eso lo que

señor maneiro usted hablaba del fracaso parcial de la republica que me ha sonado tal vez como justificación de lo que vino después

hecho estallar mis alarmas no voy ha entrar en una interpretación guerra civilista solo digo que no es

de la guerra civil sino que los crímenes franquistas se prolongaron hasta mil novecientos setenta y siete es decir hasta ayer es cierto que en este país ha habido diversos hechos de violencia diversos

política y es cierto también que el señor maneiro mientras defiende una justicia excepcional que agote castigos y que eleve

viene a avalar una justicia excepcional que olvide una legislación especial que autoamnistíe a los funcionarios franquistas que les dote de

aboga por una justicia superlativa para delitos del código penal y aboga por una justicia inhábil para delitos

humanidad y de genocidio dos elementos de calado para devolverle esa consideración que usted me ha hecho de hipocresía y

en cuanto al pp hace de la trinchera jurídica y de la falta de voluntad política su bandera porque parece ser que el pp más que

un apego especial es hacia esos perpetradores

pertenecer a su espacio político o sociológico es por eso que además de otorgarle cobertura jurídica les dan también cobijo político esto les va a causar un problema ante la comunidad internacional ya que

sin duda les va a lastrar al fondo usted señor barrio contradice a los organismos internacionales estuvo aquí mismo se hizo una reunión

y usted señor barrio se atrevió a despachar a este experto

tendrá mucho trabajo que hacer en otros países le voy a dar un dato para que vea cuál es el ranking real

estados tras camboya españa es el segundo estado en número de forzosas es un estado que ha perpetrado gravísimos delitos crímenes de lesa humanidad delitos de genocidio a los cuales ustedes les dan cobijo

otra vez manipulador ya lo hizo en el debate sobre el asunto cabacas que falseó unas cosas que yo había dicho

y que yo no defendía y ha vuelto a hacerlo hoy aquí otra vez o está sordo o es que es un manipulador evidente yo cuando hablaba de fracaso parcial no me refería al fracaso parcial de la segundo república sino al fracaso parcial del alzamiento

esto es lo que yo he dicho ojalá hubiera fracasado absolutamente ese alzamiento pero al ser o al cosechar un fracaso parcial llevó como consecuencia a la guerra civil eso es lo que yo he dicho por lo tanto no manipule mis palabras está perfectamente claro lo que yo he dicho

yo condeno los crímenes cometidos durante la dictadura y que yo soy un defensor de la democracia y de la libertad es evidente aquí el que está fuera de la democracia

usted que viene aquí en fin a defender víctimas de hace décadas cuando las víctimas de hace dos días provocadas aquí por su banda terrorista ante estas usted se mantiene

usted defiende a la banda terrorista a la banda terrorista usted no exige su disolución a la banda terrorista usted por eso usted no tiene ningún tipo de credibilidad y por eso usted es un cínico y un hipócrita y esta es la conclusión los demás somos demócratas condenamos la violencia

es insultar al resto de los parlamentarios vascos y ya esto empieza a ser absolutamente insoportable porque usted insulta la inteligencia usted que habla

usted que habla de ejecuciones qué pasa con las ejecuciones

usted que habla de las torturas qué pasa con las torturas provocadas por eta ante eso usted calla se mantiene

sino que las defiende porque usted da cobijo político

llamada eta que ha durado hasta ayer y que todavía por cierto no se ha disuelto por eso tengo que decirle otra vez que es un cínico y un hipócrita y además un manipulador

yo sí yo defiendo la ley de amnistía yo defiendo la ley de amnistía este debate lo llevó

al congreso de los diputados y le apoyaron ocho parlamentarios trescientos veinte votaron en contra

mayoría que defiende la ley de amnistía como instrumento para cerrar un determinado ciclo y avanzar en la reconciliación nacional

para consolidar la democracia y hacer posible como digo la reconciliación nacional sí yo creo en la ley de amnistía uno de cuyos objetivos por cierto ya le decía antes era

yo formo parte de esa inmensa mayoría de españoles que sigue defendiendo la ley de amnistía para garantizar

un futuro de unión entre todos los españoles y para hacer posible la reconciliación nacional

amnistiar el pasado de todos para construir un nuevo país en el que todos podamos vivir

representante en su momento del partido nacionalista vasco cuando reclamaba un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil antes de ella en ella y después de ella hasta nuestros días qué le parece la posición del partido nacionalista vasco hace pocos años cuando se

y el partido nacionalista vasco dijo que era un debate irrelevante qué le parece todas estas declaraciones nosotros evidentemente compartimos

he leído aquí parte de su discurso he leído aquí y efectivamente yo me siento reflejado como una inmensa mayoría de ciudadanos españoles en ese discurso sin ningún problema por lo tanto reivindico la transición española la ley de amnistía y reivindico también la ley de memoria histórica seguro que tiene que ser perfeccionada que seguro que tiene que ser desarrollada que seguro que tiene que provocar mayores avances y

todo esto no defiendo en ningún caso ningún tipo de impunidad defiendo la justicia

político que hubo entre españoles para hacer posible la convivencia entre todos ellos esto es lo que nosotros defendemos y está perfectamente reflejado en nuestra enmienda de totalidad evidentemente no apoyaremos

yo he expresado argumentos que se basaban en posiciones políticas en posiciones políticas y en posiciones

para nada he hablado de tiempos ni de nada ni de cambios del fundamento de esto eso ha sido una contextualización mis argumentos han ido en base jurídica y en base política pero me parece de un mal gusto lo suyo eso de traernos aquí a colación a julián besteiro y a indalecio prieto uno muerto en la cárcel de córdoba

porque no creo que en esta cámara ningún grupo parlamentario ningún partido político pueda presentar un currículum un expediente de defensa de la democracia durante la guerra civil durante toda la guerra civil del año treinta y seis al año treinta y nueve no del treinta y seis al treinta y siete durante toda la dictadura hasta el año setenta y siete y creo que ningún grupo político de esta cámara puede

un expediente como este un expediente que luego se ha prolongado hasta

siempre en defensa de la democracia y de las libertades muy mal gusto señor ramírez escudero muy mal gusto el suyo bien les voy a repetir los argumentos

nosotros sobre esta petición concreta de la extradición lo que hemos dicho

a la jurisdicción internacional porque ya se ha pronunciado la jurisdicción española en repetidas ocasiones que la jurisdicción internacional actúa cuando un estado no asume su soberanía para dictar sentencia y actuar sobre diferentes cuestiones y eso es lo que hemos dicho

que lo que ustedes dicen ya está resuelto porque hay sentencias hay declaraciones de los tribunales

español para no acceder a la extradición es un problema jurídico

para profundizar el reconocimiento de estas víctimas les he abierto y les he dicho que hay que recuperar la ley de memoria histórica porque es un instrumento capaz y posiblemente y esa comisión

espero que también lleguen a conclusiones que permita avanzar en esa ley de memoria histórica del año dos mil siete porque creemos que es una vía una vía política porque en estos casos la vía penal

exclusiva y sobre todo no suele ser suficiente cuando la vía penal cuando la vía jurídica tiene sus trabas y es lo que se está viendo actuemos en la política

que esa comisión que usted ha nombrado se ponga de acuerdo y avanzaremos y seguiremos adelante pero seguiremos adelante si nos respetamos señor ramírez escudero no si hacemos aquí

porque yo nunca he sospechado de la democracia histórica

desde el punto de vista no jurídico sino de los derechos humanos de firmar la propuesta de hoy creo que la podían haber firmado y me he referido a eso usted me ha entendido mal porque en ningún momento he querido herir

histórica democrática porque evidentemente todos sabemos que está ahí me extrañaba que perteneciendo a un partido que tuvo muchas víctimas y que estuvo en el bando perdedor no hubieran tenido hoy un poquito más mano izquierda para habernos puesto de acuerdo tres partidos en lugar de dos me refería

se ha dicho en la primera parte que había venganza que había rencores que había confrontación yo creo que aquí nadie trae ni una cosa ni la otra nadie quiere vengarse de nadie nadie quiere hacer una confrontación y tampoco nadie quiere hacer

setenta y nueve años dentro de mes y medio y ha pasado mucho tiempo pero el hecho de hablar

que no se pueda permitir o instar a un gobierno a que si una jueza argentina

delitos y ve unos presuntos culpables en base a derecho internacional intente extraditar a esas personas para tomarles declaración son casos completamente compatibles es decir los

ley de amnistía nacional estatal que haya entonces nosotros

que había que instar al gobierno de españa para que intentara

y eso puede ser incluso también compatible con el hecho de que haya habido ley de memoria histórica y también una ley de amnistía

gracias presidenta brevemente mire señor arzuaga me acusa de que me gusta la trinchera jurídica sí me gusta la trinchera jurídica

encubridor en el que usted se suele encontrar permanentemente y en casos como este vuelve a salir de manifiesto y ahora además usted es un mal jurisconsulto internacional nos amenaza supuestamente al gobierno de españa

nos amenaza con eso con consecuencias internacionales por qué por fundamentar sus acuerdos en el derecho

las opiniones y las sentencias de los tribunales no lo sé me parece que

jurisconsulto internacional es usted y usted tiene muy poca legitimidad para

y de crímenes usted no tiene legitimidad mientras usted no los condene todos la memoria histórica

usted no nos puede traer aquí estos debates exigentes no los puede traer

siga usted en ese zulo encubridor así no iremos muy lejos el señor ramírez escudero no me ha contestado a la pregunta sobre la calificación actual de arzalluz

aprobación de la ley de amnistía en su momento no me ha dicho si ahora sería un traidor en relación con el planteamiento que usted hace el nuevo planteamiento en relación con esas cuestiones no lo sé

pero no me lo ha explicado y sí me gustaría porque yo creo que hay una contradicción

entre esas cuestiones usted ha dicho que hay que analizar cómo hay que analizar

jurídico no de los derechos humanos no jurídico usted pide extradiciones y detenciones y esas son cuestiones jurídicas que tienen que aprobar definitivamente en decisiones fundamentadas en el derecho y eso es lo que está haciendo

y el gobierno de españa es decir yo me refería antes

de debates parlamentarios o de preguntas parlamentarias en relación con

muchas contestaciones se ha recordado en esos informes que españa

y se recordaba también que las leyes en vigor garantizan la protección en

de cualquier delito así como la memoria de las mismas también por hechos producidos en periodos pretéritos caracterizados por las libertades todavía esas cuestiones están garantizadas se puede avanzar

sin ningún género de dudas de otra parte se puede señalar que el extracto de las observaciones del gobierno en relación con el informe del relator especial de naciones unidas

que son pilares del estado de derecho esa declaración se produce al hilo de las consideraciones contenidas en el informe del señor de greiff sobre una supuesta interpretación restrictiva

defiende esos pronunciamientos de los tribunales españoles como no podría ser de otra manera porque están fundamentados en derecho

es básico en todo estado de derecho y no resulta incompatible además con las disposiciones del convenio de naciones unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas que entró en vigor en españa el veintitrés de diciembre de dos mil diez

con el multilateralismo y la protección y promoción internacional

órgano creado por la convención para conocer comunicaciones individuales relativas a posibles violaciones del convenio de conformidad con el artículo treinta y cinco la competencia del comité

iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente convención son

jurídicos legales son cuestiones así pero que tienen su peso y que hay que reconocerlos y que desde luego los gobiernos democráticos los utilizan para fundamentar sus decisiones y sus posiciones y con respecto a la protección y reparación de las víctimas y de sus familiares

que desde los inicios de la democracia empezaron adoptarse medidas de reconocimiento y reparación que culminaron además con la adopción de la conocida como ley de memoria histórica de dos mil siete

así como otras de carácter simbólico y también se indica que se ha

que coinciden en que el procedimiento penal no es la vía para dar satisfacción a las pretensiones de los demandantes pero ofrecen la vía contenciosa administrativa como vía correcta de acuerdo con la concepción procesal española y prevista en la ley cincuenta y dos barra dos mil siete finalmente se toma nota de las observaciones

que considera excluidas de las medidas de reparación con el fin de estudiar su encaje en la legislación vigente

que por su orientación sexual sufrieron pena de prisión en aplicación de la legislación en vigor durante el franquismo y se señala que dichas personas también tienen a su disposición la posibilidad de solicitar la declaración de reparación

cincuenta y dos barra dos mil siete es decir se sigue avanzando y se siguen tomando amaitu mesedez

aldezteko muchas gracias señora presidenta buenas tardes señorías

y voy a lo que voy bien en este caso traemos una iniciativa en la que pretendemos poner voz una vez más a lo que nos trasladan ciudadanos y ciudadanas

es muy interesante esta iniciativa a los que no acabamos de dar una solución satisfactoria vaya esto por delante porque lo que hacemos es traer aquí lo que nos ha pedido concretamente accidentes y que nosotros los socialistas y entiendo que ustedes también compartimos plenamente hoy no estamos dando soluciones suficientes a la siniestralidad en las carreteras estamos en vísperas de nuevos desplazamientos masivos por nuestras carreteras que comenzaran

las sanciones continuarán alertando de las secuelas de los accidentes y culminarán con un recuento con el que cualquier dirección de tráfico en estos momentos

depende del referente que busque pero no vale solo con esto

y con esgrimir estadísticas no vale conformarse con tener detectados los puntos negros no vale con recontar los controles

seguro que son menos que hace pocos años pero cada uno de ellos señorías deja enn el camino sus proyectos de vida de futuro y una estela de destrozos y de dolor en las personas que les rodean que no

porque las estadísticas de hoy no van a impedir que sean sustituidas por otras mañana y que ya haya remedio que valga claro que todos celebramos que los accidentes hayan disminuido en los últimos tiempos cualquier estrategia diseñada por cualquier gobierno en esta materia ha sido importante y sin duda es muy importante y determinante la mano dura contra las infracciones

y también el empeño de nuestras policías por vigilar en transito

más que imprudentes no voy a utilizar otra palabra por aquello de utilizar un lenguaje correcto en sede parlamentaria sigan conduciendo un vehículo por multar

por mejorar en la atención sanitaria de los heridos por reducir los tiempos de respuesta todo eso es muy importante y de todo eso se habla en el plan de seguridad que nos presentó el gobierno a principios de año

incluso con estas medidas un siniestro múltiple uno en un transporte público cualquier fatalidad nos cambia la estadística también lo hará seguramente la bajada del precio de la gasolina o que pueda haber indicios económicos para algunas familias que decidan animarse a viajar en carretera

reducido importantemente en los tiempos más duros de las crisis la estrategia de un gobierno no puede limitarse por tanto

lugar a una estadística benévola y algo de eso hay en el plan de nuestro gobierno lo que debemos hacer si queremos una estrategia de medio plazo

en aquello que evite no ya los accidentes de ahora y sus secuelas que también sino los próximos y aquí y como en tantas ocasiones repetimos tenemos en nuestra mano medios y competencias

a los accidentes tal y como exhibe una muy conocida cadena de televisión

no es un anuncio es la realidad que tenemos en nuestras manos señorías

empezando por la sensibilización siguiendo por la formación y estableciendo la protocolización de las actuaciones

del hecho ocasionado en vía pública y donde está implicado un vehículo por lo menos

es algo que asimilamos como algo normal como algo fortuito como algo que nos parece inevitable y en realidad hay muchas veces que con el desapego de los inconscientes solo nos afecta personalmente si nos afecta

o afecta a un familiar y solo nos afecta socialmente si existe cierta alarma eso que llega a salir en los telediarios o abre la portada de un periódico

en lo demás habitualmente es algo que llega a causar cierto morbo lo dicen las asociaciones incluso si somos observadores desde la carretera cuando nos quedamos mirando las vacas al tren

la adecuada atención a la conducción si estamos conduciendo y produciendo retenciones innecesarias o incluso nuevos accidentes

experiencia y esto es lo primero que hay que cambiar el espectáculo debe ser sustituido por la solidaridad

exige sensibilización sensibilización en los usuarios de la carretera en los profesionales que trabajan directamente para resolver los accidentes y ese es el punto nuclear de nuestra propuesta señorías la sensibilización que debe llegar a los más jóvenes a los que todavía no se han sacado ningún tipo de carné de conducir

nunca ni podrán comprobar como dice algún político ilustre que lo tiene

han sentido esa falta de sensibilización y sobre todo creen que pueden aportar mucho en la formación de los jóvenes tanto como para que sean buenos conductores como para que sean

más ciudadanos para ello y aquí la competencia propia del gobierno vasco los centros educativos tienen que ser el embrión que germine años después

pero también debemos actualizar la formación de los profesionales de la asistencia en carretera la instrucción de los accidentes en euskadi recaen en la ertzaintza y las policías locales cuando se trata de zonas urbanas

es buena y la formación también como todo mejorable y aunque siempre como digo es mejorable según constata los afectados por los accidentes de tráfico

heridos graves en zonas interurbanas e incluso en zonas urbanas

locales no tienen turno de noche disponen de pocos efectivos o no existe policía local son agentes de seguridad ciudadana y cuando esto ocurre hay deficiencias en la atención hay deficiencias en la formación hay deficiencias en la información y trato a las víctimas de esos accidentes y eso hay que solucionarlo

las capitales disponen de unidades de especialistas de investigación y de atención en accidentes de tráfico pero en el resto de las localidades los agentes son generalistas sin especialización en investigación de accidentes ni de trato

ni con sus familiares y cuando estamos hablando de esta situación estamos hablando del espacio geográfico más amplio de nuestra comunidad donde se hace imprescindible

agentes cada día acometen un sin fin de actuaciones diversas sin posibilidad de acceder a especialización por la carga de trabajo y por la amplitud de funciones y a esto hay que añadir que realizan muchas veces la instrucción de atestados por vías interurbanas que por ley debería ser función de la ertzaintza es hora en definitiva adaptar protocolos y funciones a la normativa y necesidades actuales homologando las actuaciones como también reclamamos en nuestra enmienda y en nuestra

y como les decía protocolización todos los accidentes deben ser tratados de igual forma con total profesionalidad y medios que no existan diferencias que no exista ningún tipo de diferencia dependiendo del lugar del accidente y de la policía que actúe todo absolutamente todo

desde la atención al incidente a las personas y a los familiares a la gestión del propio atestado

la gestión de pertenencias de las víctimas la gestión de los vehículos etcétera porque hay cosas

o las pertenencias que quedan dentro lo que no puede seguir ocurriendo

tengan que estar dando tumbos preocupándose de talleres o de otras circunstancias de índole menor la protocolización señorías permite sobre todo que

sepan siempre cómo es la línea de actuación y eso siempre va a reducir tiempos de respuesta y va a optimizar la atención y finalmente hay otro aspecto que es mejorable y que también está en nuestra mano

jueces y fiscales necesitan formación en esta materia esa sensibilización de la que hablan los familiares de las personas que han sufrido graves accidentes debe alcanzar a quienes van a tener que decidir sobre las consecuencias penales o civiles o las que sean de un siniestro para ser sensibles a todos los aspectos que rodean estos hechos

el alcance de las sentencias que emitan tanto en el ámbito del procedimiento judicial como en todas sus fases para que además esas resoluciones finales sean

los afectados que muchas veces no lo son hay personas que no entienden absolutamente qué es lo que se ha sentenciado o bien en un juicio de faltas en un procedimiento abreviado en el que ha habido

esto no puede ser en definitiva traemos una propuesta que quiere ir más allá de la mera contabilidad con la que medir

referidas a la siniestralidad vial queremos como dicen las asociaciones crear la cultura de la seguridad vial de la movilidad sostenible

de personas que ya han sufrido accidentes que saben lo que es un sufrimiento

un sufrimiento evitable y quieren que no se produzcan más tragedias yo creo señorías que en esta cámara estamos todos y por lo tanto estoy segura que todos y cada uno de los grupos van a apoyar la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos estoy segura y por lo tanto les agradezco de antemano que lo hagan

azken hamar urteotan por lo tanto la seguridad vial debe ser un área de actuación prioritaria y fruto de esa preocupación y del compromiso de este gobierno con las personas y tras un proceso de reflexión y análisis a lo largo del dos mil catorce se ha elaborado el nuevo plan estratégico de seguridad vial

dos mil quince dos mil veinte un proyecto muy ambicioso con el principal objetivo de reducir aún más

hay que destacar que el número de personas fallecidas en euskadi ha descendido de manera importante

respecto a las cifras de dos mil tres lo que hace que euskadi se posicione con unos ratios de siniestralidad de los más bajos de europa solo superada

e incluso los datos del pasado dos mil catorce han sido extraordinarios con un descenso del cuarenta y ocho por ciento respecto al dos mil trece constituyendo el mejor dato

y trescientos setenta y uno heridos de gravedad cincuenta y nueve menos que el año anterior no obstante como decía la señora gallastegui y lo compartimos hay que seguir trabajando en esta línea ya que no se puede permitir la pérdida de una sola vida por este motivo el plan estratégico de seguridad vial y movilidad segura y sostenible dos mil quince dos mil veinte nosotros sí creemos que aporta

y se enmarca dentro de las políticas en materia de seguridad vial tanto internacional como estatal así como las derivadas de los planes y programas transversales del gobierno vasco y lo que pretende es situar a euskadi

en el cual la ciudadanía tenga un comportamiento responsable y las instituciones públicas en colaboración con los agentes privados trabajen de manera coordinada y eficiente

y es de destacar los cinco objetivos generales que establece el plan para los próximos cinco años

mejorar la gestión del tráfico en las vías principales mejorar la seguridad vial en las carreteras secundarias corregir comportamientos inadecuados distracciones velocidad alcohol y drogas y favorecer la movilidad segura y sostenible en entornos urbanos como decía la señora gallastegui hemos llegado a una transaccional con el grupo socialista al que agradecemos

y creo sinceramente que fruto de la transaccional la propuesta resultante mejora sustancialmente la inicial en la que el primer párrafo queda como estaba inicialmente planteado por el grupo socialista y como decía la señora gallastegui lo que trata es de incidir en la sensibilización y formación encargados de administrar justicia en estos supuestos en el segundo párrafo se insta

y la labor de coordinación con las policías locales para mejorar homologar y protocolizar

como de las diferentes policías locales de euskadi en este sentido las policías locales son formadas en la academia vasca de policía y emergencias en materia de seguridad vial y de hecho

a la hora de proponer medidas preventivas en favor de la seguridad vial ya han pasado más de setenta agentes por esto cursos y se sigue impartiendo los mismos

también tiene formado un grupo de trabajo que en colaboración con asociaciones expertos y otras direcciones de gobierno trabajan por mejorar los protocolos

y desde la dirección de coordinación de seguridad se mantiene un contacto continuado con las distintas policías locales compartiendo información actuaciones y propuestas en todas las materias

incide el segundo párrafo en mejorar homologar y protocolizar todas estas actuaciones finalmente en el tercer párrafo

en colaboración con las organizaciones sociales relacionadas con la seguridad vial sigan trabajando y fomenten las actuaciones de prevención sensibilización y concienciación en el ámbito de la seguridad vial

no hay que hablar solo de competencias en materia educativa muy importantes y a ellas recoge también

pero no solo hay que hablar de materia educativa porque nos quedaríamos cortos ya que otros departamentos también pueden tener ámbitos y tienen ámbitos de actuación a favor de la seguridad vial y no podemos olvidar que la concienciación

cosa de menores tenemos que concienciar a todas las edades empezando por la base pero terminando con las personas más mayores y de ahí que los colectivos vulnerables a los que se refiere el plan los ciclistas los motoristas los peatones y las personas mayores y con cada uno de ellos es necesario realizar acciones de concienciación y sensibilización la dirección de tráfico también adquirió el compromiso en la comisión de seguridad vial de euskadi de fomentar las relaciones con las organizaciones sociales relacionadas con la seguridad vial así se denominan en el decreto de creación en este grupo nos encontramos con asociaciones de víctimas

gracias señora presidenta buenas tardes a todos la verdad es que es una lástima que esta iniciativa

en la tarde después de comer porque es una iniciativa muy interesante

del aprecio personal que sabe que le tengo señora gallastegui yo desde luego no tengo ningún empacho en que cuando la iniciativa de otro grupo me parece

interponer ninguna enmienda porque la pensaba votar tal cual sino que sí me parece que es conveniente y adecuada

de que es verdad que en todos estos años no solamente en euskadi sino también en el resto de españa

se han reducido mucho los datos de accidentes de tráfico

que cualquier accidente de tráfico aunque solo fuera uno en tanto en cuanto lleva la pérdida de vidas humanas o lesiones

es algo a lo que hay que intentar acabar con ello es verdad que los factores de riesgo

internacionalmente conocidos y que las cuestiones sobre las que hay que trabajar también es algo que todos conocemos y aunque es verdad como digo que

hablábamos esta mañana de las estadísticas pues en estos temas más que en ningún otro no nos podemos quedar en las estadísticas no podemos quedarnos satisfechos diciendo las políticas de seguridad vial están funcionando simplemente porque los accidentes están disminuyendo aunque ello suponga sobre todo no solo por los costes económicos sino sobre todo por los coste en vidas humanas

absolutamente positiva a nivel nacional pues es la dirección general de tráfico la que se encarga de estas políticas y de realizar actividades estructurales actividades

prioritarias como usted ha dicho se han introducido modificaciones en el código se modificó la ley de seguridad vial el año pasado con los dos objetivos de reducir la siniestrabilidad y también de mejorar la seguridad

y se aumentaron las sanciones porque es verdad que el aumento de las sanciones en muchos casos sirven para quien no tiene la suficiente

políticamente hablando porque estamos en esta cámara para quien no tiene la suficiente decencia como para que cuando se pone a un volante pues tener un comportamiento cívico por lo menos el miedo en la sanción hace que si no de motu propio aunque sea obligado pues tenga en cuenta las condiciones en las que se pone

no es suficiente porque esas sanciones en muchas ocasiones no son suficientes es necesario medidas preventivas y es necesario medidas formativas

y ayer mismo lo hablábamos esta mañana se aprobó en el senado que para completar esta sensibilización por parte de la televisión pública se difundiesen programas sobre seguridad vial pero aquí en euskadi como se ha dicho tenemos nuestro propio plan de seguridad vial y tenemos nuestros medios y nuestras competencias y de lo que se trata es más allá de presumir siempre de nuestras propias competencias pues que las ejercitemos que lo hagamos bien

llevar a cabo actividades formativas y de sensibilización que le corresponden al gobierno vasco para evitar

a esa visión cero que aunque pueda parecer una quimera yo creo que todos los responsables públicos debemos

a conseguir por eso yo le decía que no había interpuesto

ninguna enmienda porque me parece absolutamente adecuado todo lo que se propone y en la enmienda de transacción lo que está recogido también y desde ahora

la vamos a votar nuestro grupo favorablemente me parece muy bien la protocolización evidentemente es necesario que se actúe igual cualquiera que sea la policía y cualquiera que sea

además de para que los propios agentes que tienen que realizar los atestados para que las propias autoridades sanitarias que intervienen sepan que hacer en todo momento

o al que sufre el accidente no se le añadan mas preocupaciones mas allá de las que el sufrimiento

dicho accidente me parece bien las formaciones de fiscales y jueces porque es verdad y usted y yo que nos dedicamos a sabemos que muchas veces las sentencias y cuando

es verdad que es complicado y todo lo que sea facilitar todo esto

a los jóvenes y esas campañas de sensibilización por ello yo simplemente no voy a intervenir en segundo turno anunciar desde aquí que vamos a votar favorablemente

porque como digo el éxito de las políticas de seguridad vial

lo que tenemos primero es que intentar conseguir

en un futuro no muy lejano accidentes cero y sobre todo prevenir sensibilizar y educar

futuros de lo importante que también en la carretera es actuar con responsabilidad nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

presidenta si me permite desde el escaño con su permiso

señora beitialarrangoitia coincido con usted en que efectivamente hay que promocionar muchísimo más otro tipo de transporte transporte público etcétera etcétera hay que la movilidad sostenible una ordenación mejor del territorio y a eso ayudaría mucho mucho hablando del transporte público

a un transporte público interterritorial equitativo y en igualdad es decir que cualquier ciudadano vasco viva donde viva

dentro del territorio de euskadi no le cueste a uno veinticinco euros al mes y a otro trescientos veinticinco porque eso lo que pasa y lo que

y mucho más cómodo y eso también ayudaría esto de que al final tenemos tres territorios que cada uno decide

y en ese sentido ahí también habría una posibilidad de mejora y en cuanto a lo que me comentaba vamos a ver

el plan de seguridad vial es bueno es mejorable es insuficiente no es suficiente pero en cualquier caso señor zorrilla el problema que tiene sobre todo muchos de estos planes de seguridad vial es que establecen un porcentaje al que quieren llegar como máximo

eso porque cualquier accidente cualquiera es exactamente la constatación y la evidencia de un fracaso de cualquier política de seguridad vial no se pongan ustedes

es mucho mejor no ponerse porcentajes y llegar a más

es evitable y cualquier tipo de actuación interdisciplinar en el ámbito de la seguridad y del ámbito de la movilidad

de ordenación del territorio como hablaba la señora beitialarrangoitia es importante y el objetivo es accidentes cero es difícil sí

independientemente de lo que decía la señora gallastegui tiene que fijarse unos objetivos

de hecho el plan que normalmente son de cuatro años es de cinco porque coincide con el objetivo europeo de seguridad pues lógicamente comparto con usted el que cualquier accidente puede